euskadi necesita ponerse al día necesita responder

las demandas de igualdad en derechos y obligaciones de cohesión territorial y social las demandas de transparencia de eficiencia de garantías en la prestación de servicios públicos

escapan de nuestras manos no las excluyen aunque las exceden pero actualizar nuestro autogobierno es una de nuestras tareas hay una parte de responsabilidad que es nuestra la de ponernos de acuerdo entre los vascos y otra parte que apela al resto de españa

para mejorar ese proyecto compartido y colaborativo que ahora ya tenemos pero como decía hay cosas que solo dependen de nosotros y una de ellas es avanzar en la modernización y en la racionalización de nuestras administraciones

una propuesta para la modernización de nuestra organización institucional interna

y eso es lo que proponemos hoy a esta cámara le proponemos que sin esperar a nadie sin depender de nadie más que de nosotros lleguemos a un acuerdo renovado de colaboración y cooperación entre las distintas administraciones vascas un acuerdo que permita que esas administraciones sean más eficaces prestando servicios públicos y garantizando derechos a los ciudadanos y que desde la diversidad territorial y el reconocimiento de las diferencias entre los territorios la colaboración permita que los ciudadanos

eso supondría reformar la constitución y el estatuto y no lo hacemos en esta proposición el estatuto reconoce a los territorios históricos y su capacidad de organizarse por supuesto pero también reconoce a euskadi a la comunidad autónoma una serie de competencias que afectan al conjunto de los vascos durante treinta años

esa distribución de responsabilidades en función de lo que el propio estatuto dice en las materias que el parlamento le señale y esa ley no tuvo precisamente un gran consenso

nuestra sanidad nuestra educación nuestra protección social nuestra normalización lingüística o las de reconocimiento de las víctimas aquella ley fue polémica

ha perdurado durante tres décadas y lo ha hecho con modificaciones puntuales porque aquel diseño chocaba en muchas ocasiones con el desarrollo del resto de la legislación

la ausencia de una ley municipal propiciaba que ese reparto funcionara como una especie de organización interna convenida hoy estamos trabajando por fin una ley municipal una ley que va a definir las responsabilidades que deben asumir nuestros ayuntamientos

y las compensaciones que deben existir cuando por distintas razones se producen desequilibrios

el conjunto de nuestra arquitectura institucional un compromiso asumido por el propio gobierno en los acuerdos que suscribió el lehendakari en septiembre del dos mil trece con mi grupo parlamentario llegamos a ese acuerdo tras haber escuchado en la ponencia de duplicidades una gran mayoría

pusimos un plazo para hacerla pero el gobierno y el partido que le apoya no han cumplido su parte por eso no se puede despreciar que este grupo parlamentario y no el gobierno haya asumido la responsabilidad de traer esta ley pero los socialistas hacemos valer una vez más

la hacemos valer como hicimos los socialistas en solitario con la ley de incompatibilidades

las suyas por tanto no cabe pretender desdibujar esta propuesta ni por la autoría de la iniciativa ni porque desvirtúe lo previsto por el estatuto ni cabe apelar a conceptos que se han mitificado partiendo de falsedades y me estoy refiriendo al llamado núcleo intangible de la foralidad

como tal como hemos visto en muchas alegaciones que han presentado las diputaciones forales instituciones forales que los son porque es la constitución la que reconoce y ampara la actualización de los derechos históricos pero es el estatuto el que actualiza

que todo eso dice la disposición adicional primera no solo nos debemos quedar en la primera frase porque euskadi históricamente se ha articulado en los regímenes forales y fue la constitución del setenta y ocho primero y el estatuto de gernika después

pero de forma singular en el nuevo sistema autonómico las instituciones comunes son las receptoras de la actualización foral es pues el estatuto de autonomía el que concreta los términos de aquella actualización y así lo aclara el tribunal constitucional en su sentencia del año ochenta y ocho

y se convierte por tanto en norma fundacional de las instituciones comunes como también en norma de integración y reestructuración

otra cosa es que después de aprobado el estatuto se haya pretendido otra evolución de la articulación institucional interna que se haya pretendido exclusividad de los territorios históricos en un importante ámbito de competencias o que en el marco del concierto económico se haya querido convertir a las instituciones comunes en convidadas de piedra o que se haya querido implementar un sistema confederal en la distribución de los recursos financieros

a través de las leyes insisto es el estatuto a partir del marco que permite la constitución el que desarrolla la capacidad de nuestras diputaciones

la garantía institucional del sistema foral reserva

unas competencias mínimas fundamentalmente vinculadas a esa garantía y establece que más allá de ese ámbito mínimo a los territorios históricos les corresponderán las competencias exclusivas que les sean transferidas por las instituciones comunes

les señale por eso lo que plantea esta propuesta es perfectamente encajable en nuestro estatuto por eso decía que no necesita de nada más ni de nadie más que de la voluntad de los que nos sentamos en este parlamento es una propuesta que reconoce el importante papel que debe corresponder a los territorios históricos en la gestión

de la actividad pública pero que reconoce a la vez que la dirección política global corresponde a este parlamento y al gobierno vasco

la larga tradición de gestión de las diputaciones forales consolidándolas como entes supramunicipales de gestión de importantes servicios públicos y parece conveniente

pero se trata también de reforzar sobre todo la integración política a través de la atribución de las facultades de dirección política al gobierno vasco

porque una comunidad autónoma de las dimensiones de euskadi que son las de una gran ciudad no puede permitirse tal disgregación política como la que se ha ido

y si vamos al punto de vista tributario la existencia de tres sistemas competenciales para fijar las normas se ha mostrado un anacronismo que deja a este parlamento

porque la unidad de regulación en un ámbito tan reducido como euskadi es ineludible porque la reserva de ley es un requisito ordinario en todos los sistemas democráticos y porque es necesario el ejercicio de la dirección política común por parte del parlamento vasco y del gobierno vasco sobre todo cuando el setenta por ciento de todo lo que se recauda es el grueso con el que se financian los servicios públicos para el cien por ciento de la población

no deberíamos de tener también capacidad de decidir cómo se obtienen esos ingresos la reforma que proponemos no afectará al sistema de gestión de los tributos

estructura de la hacienda pública la modificación se limita a garantizar la armonización a nadie de esta cámara le puede sorprender es lo que hicimos en septiembre del dos mil trece desde la insistencia socialista en un pleno monográfico y que dio lugar a las tres reformas fiscales en los tres territorios con criterios homogéneos y porque además

ya viene limitada por la ley del concierto y del estatuto desarrollados en la ley de armonización y a pesar de esa capacidad reconocida históricamente ha habido

porque los territorios han ido imponiendo de hecho la marginación de la competencia armonizadora de las instituciones comunes esto lo hemos ido corrigiendo con mucha voluntad política como he dicho sentando las bases en este parlamento de las reformas aprobadas por las tres juntas generales

que se han querido fijar sobre las intenciones de esta ley estos son los objetivos primero modernizar el entramado institucional interno de esta comunidad autónoma

queremos avanzar hacia un modelo institucional más sostenible y eficaz clarificando el reparto competencial estableciendo mecanismos de coordinación y de cooperación

garantizar la igualdad y la cohesión social y territorial que todos los vascos vivan donde vivan tengan los mismos derechos las mismas obligaciones prestaciones y acceso a los servicios básicos proponemos que los desequilibrios se corrijan con un fondo especial para la nivelación territorial

mejorar la calidad democrática y la transparencia de nuestras instituciones queremos devolver al parlamento vasco el papel que le corresponde en la orientación política general de euskadi que ejerza las potestades tributarias que derivan del estatuto de autonomía que participe en la distribución de los recursos financieros

se decida entre todos los que aquí representamos a todos los ciudadanos vascos y por último un eje fundamental de este proyecto es el de sostener los servicios que prestan los ayuntamientos

queremos garantizar a los municipios los recursos suficientes para ejercer las competencias y que el parlamento vasco determine los criterios de reparto

esos presupuestos anuales municipales esta es una propuesta de los socialistas pero con voluntad de que sirva a todos los vascos y que por tanto consiga el máximo consenso de los vascos planteamos una ley nacida sin acuerdo que ha quedado superada por la realidad y por el paso del tiempo sea sustituida por una nueva voluntad de acuerdo entre nosotros para ganar en colaboración y eficacia útil para los ciudadanos

como si la actual forma de organizarnos fuera la mejor sabemos también que quienes querrían

acabara en tabla rasa en una centralización absoluta del país con la aniquilación de las diputaciones pero ignorar o diluir la diversidad socio económica y política territorial sin reflejarla en nuestro sistema institucional sería ilusorio o aún peor la apuesta por un sistema de gobierno abocado al absoluto fracaso

creemos que hay que responder a las singularidades de los distintos territorios que la pluralidad y la diversidad deben ser reconocidas e integradas en el proyecto común que debemos actualizar

hacerlo con amplios consensos ganar en cohesión social y territorial es uno de los principales retos que tenemos que afrontar podemos dejarlo todo para después para cuando vengan otros para tiempos futuros pero eso no es lo que conviene al conjunto de los vascos

que no se pierdan sus impuestos por ineficiencias o por duplicidades nuestra obligación es dar respuesta a esa reclamación ciudadana tenemos posibilidades de encontrarnos porque no queremos dudar de que todos los grupos de esta cámara también buscan esa misma eficacia eficiencia así que pedimos a esta

para que esta propuesta sea asumida como una base de trabajo para un consenso básico sobre el funcionamiento de nuestras administraciones para las próximas décadas

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos voy a votar a favor de la toma en consideración de esta

con lo realizado en este parlamento por upyd desde que aparecimos allá por el año dos mil nueve a nadie se le escapa que ha sido upyd el partido político que en mayor número de ocasiones ha insistido en la necesidad de proceder a una reforma profunda de la ley de territorios históricos han sido innumerables las ocasiones en las que hemos defendido una iniciativa semejante han sido

mociones de todo tipo tanto a este gobierno como al gobierno anterior la solicitud reiterada permanente de

de la ley de territorios históricos por lo tanto una vez que el grupo socialista ha presentado esta proposición de ley evidentemente votaré a favor de ella y efectivamente voy a defender las mismas cuestiones y los mismos objetivos que he venido defendiendo durante todos estos años casi siempre en absoluta soledad

sobre su predisposición a impulsar esta reforma de la ley de territorios históricos e innumerables las ocasiones todas ellas en las que tanto un lehendakari como el otro

respondían permanentemente que no el objetivo por lo tanto de esta reforma de la ley de territorios históricos en nuestra opinión debe ser simplificar y disminuir el sobredimensionamiento de administraciones existentes en euskadi no tanto filosofar sobre la materia o plantear

o hacer llamadas a la reflexión y a la toma de conciencia sino sobre todo actuar modificar las leyes y modificar en este caso la ley de territorios históricos

burocratización inasumible duplicidades administrativas

y muchísimo gasto superfluo se trata de garantizar la igualdad de prestación de servicios a toda la ciudadanía independientemente de su lugar de residencia en la comunidad autónoma vasca se trata de que el ciudadano pueda distinguir con claridad los diversos niveles institucionales sabiendo exactamente cuál es la institución que le presta los servicios y a quién paga los impuestos

con absoluta claridad se trata de facilitar la prestación de más y mejores servicios públicos se trata de racionalizar y modernizar nuestra arquitectura

y clarificar el reparto competencial entre diputaciones y gobierno y de garantizar la máxima igualdad posible tanto en la prestación de servicios públicos como en el pago de impuestos lurralde historikoen legearen erreformak

eman hauek dira helburuak dicho esto y ciertamente es una realidad que

uno de los asuntos esenciales que ha venido defendiendo upyd pensamos que en el futuro inmediato es decir cuanto antes habría que ir

de lo que hoy se plantea a día de hoy lo que nosotros defendemos es una reforma profunda de la constitución española y una reforma profunda del estatuto que implicaría la propia supresión de las diputaciones de las diputaciones provinciales y también de las diputaciones forales y consecuencia de ello de las

en ese nuevo escenario al que aspiramos llegar cuanto antes es obvio que la ley de territorios históricos ya dejaría de tener ningún sentido

diputaciones y por lo tanto lo que nosotros planteamos es que antes o después tienen que llevarse a cabo esas reformas y por lo tanto no solamente o en el corto plazo la reforma de la lth sino directamente su derogación esto es lo que nosotros también de una forma o de otra hemos defendido durante estos años parlamento en ese sentido ciertamente la propuesta socialista se queda corta pero en todo caso mientras no vayamos alcanzando esos objetivos que

es necesaria la modificación de la ley de territorios históricos para alcanzar todos esos objetivos dicho esto

y se registra y se defiende voluntariamente tarde es tarde queda menos de un año para el fin de la legislatura y parece evidente que no va a haber tiempo suficiente para que durante los próximos meses se llegue a un acuerdo entre los principales partidos políticos y se apruebe reforma que el grupo socialista propone por lo tanto nuestra sospecha es clara pensamos que detrás de esta presentación de esta iniciativa en el mes de noviembre del año dos mil quince habría un pacto político entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi realmente no pueda llevarse a cabo y todo siga más o menos como está porque ya digo han sido innumerables las ocasiones en las que un servidor ha defendido en este parlamento

todos los partidos también el grupo socialista votó en contra ahora se presenta cuando falta menos de un año para el fin de la legislatura y cuando todo el mundo sabe perfectamente que no hay tiempo suficiente para llevar a cabo esa reforma en todo caso

nosotros ya digo que vamos a votar a favor de su toma en consideración para que podamos trabajar lo más diligentemente posible y podamos impulsar esa reforma de la ley de territorios históricos aunque insisto nuestro objetivo va mucho más allá nuestro objetivo es reformar

nuestro objetivo es suprimir las diputaciones provinciales nuestro objetivo es suprimir las diputaciones forales nuestro objetivo es suprimir las juntas generales de los territorios históricos

la máxima igualdad posible de los ciudadanos españoles y la máxima igualdad fiscal y todo ello con el objetivo de garantizar el mayor bienestar posible al conjunto de la ciudadanía por lo tanto a pesar de que nuestro objetivo sea ese a día de hoy pensamos que es

necesario que debatamos cuanto antes sobre este texto y podamos impulsar para mejorar la ley de territorios históricos

haber escuchado a la señora mendia defender algunos principios que nosotros venimos defendiendo durante los últimos años la señora mendia ha defendido

de los ciudadanos vascos la señora mendia ha defendido que la acción política global que afecte a los ciudadanos vascos corresponda al parlamento vasco la señora mendia ha hecho un alegato en contra de la disgregación política

ha defendido la igualdad fiscal en euskadi y ha criticado que existan tres sistemas fiscales diferentes dentro de la comunidad autónoma vasca la señora mendia cohesión territorial señora mendia y señores socialistas serían ustedes capaces de defender estos mismos principios para el conjunto

todos los vascos vivan donde vivan deben recibir los mismos servicios y tener los mismos derechos pueden llegar ustedes a decir que todos los españoles vivan donde vivan deben recibir los mismos servicios y tener los mismos evidentemente nosotros defendemos esos mismos principios tanto en euskadi para el conjunto de españa es una cuestión de coherencia igual que nos parece absurdo que haya tres políticas fiscales en euskadi nos parece absolutamente absurdo e injusto que existan cinco regímenes fiscales

o que haya dos sistemas claramente diferenciados como son el concierto económico o el convenio navarro en todo caso es un problema que tienen los socialistas ese problema de la incoherencia evidente nosotros somos coherentes y todos estos principios los defendemos tanto para los ciudadanos vascos

españoles en todo caso votaré a favor saldrá adelante y podemos decir que seis años y medio después

y procedamos a la reforma de la ley de territorios históricos en el caso upyd sin olvidar cuáles son sus objetivos superiores que es garantizar la máxima igualdad del conjunto de los ciudadanos vascos del conjunto de los ciudadanos españoles para lo cual es indispensable como decía antes una reforma profunda de la propia constitución española es un paso necesario pero es un paso

gracias señora presidenta egun on guztioi evidentemente y dado el turno en el que intervengo está claro que el partido

de esta proposición como paso previo y además se ha referido la propia proponente evidentemente que los grupos políticos tenemos la

choca que el propio partido socialista cuando estaba en el gobierno decía que modificaciones importantes como sin duda

de la manera en la que se regulan los proyectos de ley es decir acompañados de todos los requisitos exigidos para la elaboración de disposiciones de carácter general y sin embargo parece que como digo en una ley

parece que esa preocupación que se tenía cuando estaba en el gobierno ahora desde la oposición no se comparte bien dejando al margen la forma de hacerla e introduciéndonos ya en el fondo es verdad que como se señala

la estructura institucional de euskadi es compleja es verdad que es a diferencia de la organización diseñada por la constitución en el resto de españa donde

el gobierno central las comunidades autónomas los territorios históricos y los ayuntamientos esta arquitectura institucional

que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales y que

es por tanto la constitución la base y la garantía de la existencia del régimen foral un régimen de autogobierno territorial propio de cada territorio histórico y es el estatuto

además de reconocer su existencia consagra su contenido mínimo el propio tribunal constitucional en diversas sentencias como por ejemplo la setenta y seis barra ochenta y ocho establece

a establecer es que tanto los poderes y atribuciones que se confieran a los nuevos órganos

instituciones comunes tienen que hacerse sin menoscabo de la garantía del régimen foral y de las inherentes competencias de los territorios históricos y como decía

viene a establecer una serie de competencias exclusivas no sé si el núcleo intangible de la foralidad señora mendia pero sí un núcleo indisponible tal y como señala el propio tribunal constitucional

establece una serie de competencias que las comunidades autónomas pueden otorgar bien a través de la ley de territorios históricos bien a través de otras fórmulas también es precisotener en cuenta que las competencias que el artículo cuarenta y uno del estatuto y la ley del concierto otorgan en las relaciones de orden tributario entre el estado y el país vasco se otorgan precisamente

desde el grupo popular queremos remarcar como lo hemos hecho en otras ocasiones nuestro absoluto respeto con la arquitectura institucional que aparece diseñada en nuestra constitución y

y si se quiere una arquitectura institucional diferente lo que se deberá abordar precisamente es esa modificación estatutaria y constitucional

con la mira puesta en el interés público sí de acuerdo con esto

siempre desde el respeto a esa estructura institucional nunca nos hemos negado desde el grupo popular a mejorar nuestro sistema institucional o a modificar la ley de territorios históricos que como cualquier otra ley

y puede ser modificada para evitar duplicidades o para evitar que unas mismas competencias sean ejercidas por múltiples instituciones a pesar de que algunas modificaciones que se han hecho

con el apoyo del partido socialista pero bien como decía la modificación

de la ley de aportaciones es decir de la que regula la distribución de recursos de euskadi derivados de la gestión del concierto económico

vaya acompasada con la distribución de competencias cosa que en este momento no ocurre en el parlamento vasco hemos trabajado en la ponencia de duplicidades del que falta

el partido socialista de euskadi ha presentado esta reforma de la ley de territorios históricos como decía al principio a través de una proposición de ley

que acusan al partido popular de ser un partido centralista sin embargo son otras fuerzas políticas las que están demostrando que les ha atacado un absoluto virus centralizador y desde luego en el caso del partido socialista además de centralizador uniformador

en el que euskadi pasaría a ser un estado federado y parece que si la idiosincrasia propia con la que contamos en este momento y una buena prueba de ello es esta proposición de ley que vamos a perder esa idiosincrasia y es esa la intención y por eso

se pone de manifiesto que lo que se pretende con la misma es que euskadi funcione como un solo país se señala también que se pretende la igualdad de todos los vascos y lo ha repetido hoy aquí

porque consideran que el mantenimiento de tres sistemas competenciales provinciales sobre la regulación normativa de los tributos se ha mostrado como un anacronismo que deja al margen las instituciones comunes en la regulación ordinaria de los tributos eso lo han dicho

esta proposición no pretende reformar la ley de territorios históricos su objetivo no es otro que centralizar las competencias lo que pretende es una pérdida de las competencias de los territorios históricos pretende

lo que persigue es vaciar de contenido propio a los territorios forales en toda la propuesta se plasma una obsesión por la fiscalización y la armonización por parte del gobierno vasco y en la propia estructura del texto se refleja

sistemática de la actual ley de territorios históricos que claramente clasifica las competencias exclusivas de las comunidades autónomas

el contenido de la propuesta es absolutamente asistemático y además de forma intencionada y va precedido de un apartado de principios generales en las que se plasma claramente

central en materia tributaria y yo diría que cuasi exclusivo así en esos principios generales señala que las competencias de los territorios históricos en ningún caso podrán menoscabar las competencias legislativas de las comunidades autónomas da igual que sea competencia exclusiva o no

legislativa para las competencias exclusivas habla de capacidad de regulación normativa qué es esto señora mendia solo la posibilidad de elaborar reglamentos

en coherencia con lo elaborado por las comunidades autónomas la potestad normativa de los territorios históricos parece solo pervivir en el caso de la competencia tributaria sin embargo se hace una regulación profusa de la armonización fiscal señalando que los territorios históricos regularán

uniforme los elementos sustanciales de los distintos tributos y que además el gobierno vasco vigilará que ello se haga así es más cuando se modifique un tributo

que se rompe esa regulación cuasi mimética del tributo elaborará un proyecto de ley de armonización que se aprobará en este parlamento vemos por tanto una clara restricción casi hasta la aniquilación de la capacidad normativa de los territorios históricos contraria a la propia normativa

tampoco casa bien con la capacidad competencial de los territorios históricos la atribución al consejo vasco de finanzas

de un plan de lucha contra el fraude fiscal eliminando esta posibilidad a los territorios históricos o ese consejo de cooperación que operará en todas las competencias

los mismos instrumentos contables así como tampoco ese fondo de nivelación interterritorial por último en la distribución de los recursos

utilizando un concepto etéreo el gasto medio por habitante que no se sabe muy bien lo qué es y además parece que se puede imponer el criterio del gobierno vasco contradiciendo lo que ha venido a decir el propio tribunal constitucional que señalaba que era necesario que la distribución de los recursos fuera fruto de un acuerdo de voluntades con relación a las competencia reconocidas en la actual ley de territorios históricos bien por formar parte

bien por haber sido transferidas y que ya por tanto pasan a ser competencias de los territorios históricos vemos que con esta nueva regulación

no estamos por tanto y esa es la fundamental razón

no estamos ante una reforma de la ley de territorios históricos no estamos ante una nueva organización del edificio institucional en euskadi y además ustedes lo han dejado

un intento de vaciar las instituciones forales con la excusa de la modernización

que nuestro sistema de concierto y de cupo se justifica por la existencia de los territorios históricos que si estos desaparecen o se vacía su contenido probablemente el concierto y el cupo serían cuestionados porque atacar a los territorios históricos

y ello no puede hacerse a través de una ley en el parlamento vasco ello si se quiere hacer

estatutaria y en su caso de una modificación constitucional como decía es por esto por lo que vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición porque

sobre la modificación o sobre la pervivencia de los territorios históricos no esta

en euskadi y a darle una estructura institucional nueva como paso previo a la desaparición definitiva de los territorios históricos y de las diputaciones forales

absolutamente respetuosos con el entramado institucional actual apostamos por su mantenimiento por el mantenimiento del gobierno vasco y por el mantenimiento de las tres diputaciones forales y por la defensa de los mismos nosotros pusimos de manifiesto y volvemos a poner hoy aquí de manifiesto que claro que se puede modificar la ley de territorios históricos

esta proposición o para finiquitar nuestros derechos históricos que es lo que pretenden algunos y bien claro ha quedado puesto de manifiesto aquí por el señor maneiro sino con el fin de mejorar la distribución competencial y de evitar duplicidades

para ir cediendo y focalizando en la construcción yo no sé si ustedes también se van a apuntar al mismo concepto de la nación foral

desde el grupo popular estamos dispuestos a pactar cualquier mejora pero que sea eso una mejora

para hacerlo más eficaz para beneficiar al conjunto de los vizcaínos pero desde luego sin atacar al núcleo sustancial de la foralidad que es lo que se hace con esta proposición porque claramente lo hace lo que intenta es vaciar las competencias propias y sustanciales de los territorios históricos y nosotros

no vamos a ir por ese camino vamos a votar como digo de cualquier aniquilación del sistema foral y desde luego yo quiero decir desde aquí que si se tomara en consideración esta proposición de ley quien debiera de reaccionar quien debiera de reaccionar deberían ser las diputaciones forales porque a quien se menoscaba su competencia a quien se quiere las competencias que en este momento tienen son a las diputaciones forales debieran de reaccionar y si

de verdad responden a los intereses de los vizcaínos de los alaveses y de los guipuzcoanos a la defensa de los territorios históricos y la foralidad debieran reaccionar si desde luego

señora llanos por elevar el tono uno no tiene más razón pero

si estamos de acuerdo en que este es un estado de derecho y que son

y el tribunal constitucional quienes resuelven los conflictos e interpretan nuestras normas sorprende su posición de empecinarse continuamente

las sentencias del tribunal supremo y del tribunal constitucional y desde luego también escuchándola he comprendido por qué ustedes

al patrón reformista y también decirle que me llama la atención señora llanos

por razones políticas que no se haya molestado en leer la propuesta federal del partido socialista obrero español porque esa propuesta

integra y mantiene las singularidades territoriales y busca sobre todo solucionar los problemas que tenemos no acabar con aquello que funciona que es por ejemplo el concierto económico decía hace poco escribía un parlamentario de su grupo que se sienta

sin foralidad no había proyecto común vasco y que no había una alternativa viable a la foralidad

sin embargo los socialistas creemos que la comunidad política de euskadi nace del reconocimiento de la ciudadanía de personas con derechos y obligaciones recogidos en la constitución y de la voluntad política derivada de esos derechos para conformar un proyecto compartido que incorpora nuestra singularidad hubo fueros en el antiguo régimen no había euskadi hubo fueros también en la restauración y tampoco hubo euskadi

a través del concierto pero tampoco existía euskadi quedó el concierto en dos provincias durante el franquismo y tampoco hubo euskadi hay euskadi cuando los ciudadanos de álava de bizkaia y de gipuzkoa deciden conformar una unidad política que reconoce iguales derechos y obligaciones y actualiza

en lo que así establezcan esos ciudadanos y esto es lo que opinamos los socialistas y esto es lo que ha sido ratificado por el tribunal constitucional en la sentencia del año ochenta y ocho

que no reconoce lo establecido por el constitucional lo cual sorprendería bastante por seguir con las sentencias que suponemos acata el partido popular debería conocer bien lo que dictó en julio pasado el tribunal supremo ratificando para álava

recuerda de nuevo el supremo que los territorios históricos no tienen competencias sobre materias presupuestarias

es competencia exclusiva de las instituciones comunes según el artículo diez del estatuto y este deja en su artículo treinta y siete a los territorios las demarcaciones los bienes municipales régimen electoral y asistencia técnica punto de dónde puede surgir esa idea de tutela foral a los ayuntamientos pues como en casi todo lo referido a la lth

un tópico alimentado solo por la práctica y por la inexistencia de la ley municipal la lth se ha venido a situar como la fórmula con la que cubrir según interpretación interesada lo referido a la regulación de lo local y esa interpretación ha sido la excusa perfecta indefinidamente hacer una ley municipal pero ya estamos por fin trabajando en esa ley con un proyecto del gobierno que por cierto sigue asomando ese paternalismo foralista

reclamaron al proyecto que hizo el gobierno socialista y que quiero recordar fue desestimado por la comisión arbitral

creo que nunca le gusta incumplir la constitución pero la propia discusión de esa ley hace aún más pertinente que revisemos la forma en la que nos organizamos internamente hoy en esta legislatura y el estatuto fija también en su artículo cuarenta y dos que es el parlamento el que determina las aportaciones de las diputaciones

deja en manos del consejo vasco de finanzas lo que decide un órgano que no es de representación directa se somete a votación sin posibilidad de enmienda ante este parlamento

nosotros queremos que esta cámara cumpla con la función que le atribuye directamente el estatuto de autonomía y cuesta entender que en este parlamento haya quien quiera renunciar a esa capacidad

esas aportaciones cómo conseguir ese equilibrio entre los esfuerzos que realizan los contribuyentes de cada territorio y cómo corregir los desequilibrios hace casi cinco meses este parlamento aprobó una ley de derecho civil foral vasco por unanimidad una ley que

lo hace para conseguir efectividad en la regulación de lo cotidiano y avanzando en la igualdad de derechos de todos los vascos con independencia de su lugar de residencia de su capacidad económica de su sexo o de su ideología

para los operadores jurídicos y para los ciudadanos no hay desgarros foralistas y se gana en eficacia e igualdad en el ámbito privado por qué no va a ser posible en lo público

dejar a un lado tabúes y complejos los ciudadanos esperan de nosotros eficacia en la prestación de servicios que es lo que hacen las distintas administraciones rechazan que perdamos el tiempo en disputas estériles que no resuelven sus problemas

pero nuestra responsabilidad en esta cámara no es la de ser historiadores sino la de resolver los problemas de los ciudadanos vascos responder y preparar este país porque
nosotros sí creemos que somos tres territorios pero un solo país eskerrik asko responder al reto del futuro que tiene euskadi que es muy grande

sí gracias presidenta señora mendia yo no creo que seamos tres territorios históricos

somos una comunidad política de ciudadanos libres iguales que conforman en este caso una comunidad autónoma dentro de un país que se llama españa creo que son cosas

ciudadanos yo no soy un territorio histórico ni somos nosotros tres territorios históricos somos ciudadanos a los que hay que garantizar derechos y servicios públicos y esto tiene que ser el objetivo fundamental de toda acción política de toda ley reforma legal de toda decisión que se tome desde cualquier gobierno objetivo garantizar mejores servicios públicos al conjunto de los ciudadanos y en este caso es ciertamente curioso

es habitual el discurso no solamente ultraforalista de la señora llanos sino

porque ciertamente ha llamado la atención que usted de las diputaciones forales como si fueran personas de carne y hueso que estuvieran de aquí para allá como si usted respetara más

que a los propios ciudadanos vascos a los que debemos servir y ciertamente llama la atención que usted defienda más a las diputaciones que a los ciudadanos y sus propios derechos olvidando que lo que toca defender son los servicios públicos la prestación de servicios

la solidaridad y que las instituciones cualquier institución cualquier gobierno es no un fin en sí mismo un medio para garantizar todo lo anterior por lo tanto cualquier reforma legal lo que tiene que garantizar no es la supervivencia de una determinada institución

concreta de las diputaciones forales ese no tiene que ser el objetivo de cualquier modificación legal sino que tiene que ser proteger a los ciudadanos garantizar que haya más igualdad mejores servicios públicos más solidaridad que la gente pueda vivir mejor por lo tanto

y céntrense ustedes en ello en qué hacemos para garantizar que la

mejor ese es por lo tanto el objetivo la señora mendia no ha querido responderme a ninguna de las preguntas porque

pero es interesante este debate más allá de analizar específicamente lo que propone la proposición de ley es interesante que aquí el grupo socialista

que disfrutemos todos de los mismos servicios independientemente del lugar donde residamos que recibamos todos las mismas prestaciones independientemente de que seamos vizcaínos guipuzcoanos

o que recibamos todos la misma financiación es interesante que ustedes puedan decir eso ojalá puedan defender estos mismos principios para el conjunto del país del que somos ciudadanos porque cuando un servidor ha defendido esos mismos principios y ha hablado de igualdad de mismos derechos de mismos servicios

usted o los que se sientan más o menos cerca de usted

de defender la uniformidad y ciertamente nosotros no defendemos la uniformidad nosotros defendemos la máxima igualdad posible y esto es profundamente progresista es profundamente progresista defenderlo para euskadi pero es también

defender estos mismos principios para el conjunto de españa

ese salto adicional que es lo que lleva defendiendo upyd en todo caso ya digo es un paso pero es insuficiente no basta con reformar la ley de territorios históricos hay que derogarla

euskadi una comunidad autónoma de apenas dos millónes de habitantes tenga cuatro parlamentos tenga cuatro gobiernos tenga tres políticas fiscales distintas

tenga un consejo vasco de finanzas tenga un órgano de coordinación tributaria tenga una comisión de lucha contra el fraude fiscal esto es un disparate y antes o después habrá que cambiarlo y hay que cambiarlo no para defender ninguna institución o para ir en contra de ninguna institución en concreto sino para defender el progresismo que nosotros defendemos máxima igualdad y más bienestar para los ciudadanos señora llanos

y hable de ciudadanía no nos hable de las diputaciones eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko llanos andrea zurea da hitza

gracias de nuevo señora presidenta señor maneiro mire

modernos antiguos de verdad lo que es antiguo es precisamente esa catalogación y lo que es antiguo es decir

reconocido en la constitución reconocido en la constitución sin embargo por defender ese entramado institucional no defendemos a los ciudadanos yo no sé la diputación foral de bizkaia de álava y de gipuzkoa

no sé si es que están en marte y es a los marcianos a los que presta esos servicios

como el gobierno vasco como los ayuntamientos como el gobierno de españa se dirige a los ciudadanos

pero usted por lo menos lo dice claramente y estos señores de aquí aunque intervendrán en explicación de voto

ese entramado institucional actual pero no se preocupe

a lo mejor de derecho no desaparece con esta proposición de ley el entramado institucional actual pero de hecho créame que sí créame que sí porque son están tan desvirtuadas las competencias y yo me he leído tenemos una comparativa

y aniquila de tal forma las capacidades y las competencias propias de los territorios históricos con ese virus centralizador y uniformador al que yo me refería

y lo que no se puede hacer es ir como tantas veces quiere ir el partido socialista

el entramado institucional actual lo que tiene que hacer es decir que no quiere que haya diputaciones forales

nominativamente y quitarles el poder eso sí sin referirse en absoluto a la distribución de recursos

yo lo que no entiendo a parte de esa actitud jacobina que tiene el partido socialista ustedes pretenden que recaude la diputación y que luego el setenta por ciento como hasta ahora se lo den al gobierno vasco y ahora ya tampoco

cómo se tiene que recaudar ni cómo se puede normar esa recaudación porque eso le corresponde al parlamento vasco mire no le voy a decir porque queda muy grosero pero a eso se le llama poner la cama

aquí hacen el trabajo otros y luego la distribución la hace el parlamento vasco contraviniendo porque si decide el parlamento vasco a quien contraviene es al tribunal constitucional que le diré que establece

que lo que tiene que hacerse es consensuar que se tiene que acordar que una institución por sí misma no puede determinar el acuerdo de la distribución de recursos

sino en el parlamento vasco y yo

claro que es incoherente claro que es incoherente la postura del partido socialista porque cuando aquí hace

estábamos debatiendo del concierto económico el señor pastor decía que se confunde

y que se puede mantener perfectamente la igualdad de los derechos de los ciudadanos sin que estos sean absolutamente uniformes señor pastor dígaselo a la señora mendia dígaselo a la señora mendia porque usted aquí ha venido a hablar de igualdad de los ciudadanos y ha venido a decir que eso solamente se puede garantizar

si la normativa propia específica y exclusiva según el estatuto y la constitución

los territorios históricos tiene que ser mimética porque si no es mimética si no es igual en los tres territorios si no está absolutamente armonizada claro porque ustedes

porque en vez de recortes ustedes hacen ajustes y entonces en vez de igualar hablan de armonizar pero bueno en el fondo ustedes

mimética y solo con esa regulación mimética se garantiza la igualdad de los ciudadanos

que no nos hemos leído la modificación del estado federal si quien tiene mucha paternidad en esa reforma que ustedes presentan aquí ha venido a decir que el concierto no cabe en la españa federal que el concierto no cabe en la españa federal quien tiene la paternidad mucha de la paternidad del documento que ustedes nos han traído aquí otra cosa es que ustedes nos van diciendo las cosas a plazo

a la vuelta de la esquina claro van sacando las cartas cuando les interesa

ahora décimos que se mantienen los territorios históricos nadie sabe para qué porque se le privan de sus competencias y dice que no respetamos

pero si es que es el propio tribunal constitucional el que viene a decir que

foral y las inherentes competencias de los territorios históricos que el mismo estatuto determina

es el que viene a decir que se tienen que garantizar las competencias de los territorios históricos porque está recogido en la constitución y ustedes se lo saltan miren si no tienen votos suficientes para modificar el estatuto si no tienen votos suficientes para modificar la constitución

porque eso es lo que ustedes pretenden modificar

no vamos a cooperar en ello no sé qué va a hacer el partido nacionalista vasco igual también como quiere

porque sino la verdad es que debieran de atender debieran de atender a lo que el señor esteban dijo cuando

que precisamente se presentaba la enmienda a la totalidad porque no respetaba la foralidad y no respetaba los derechos históricos pues yo no sé si van a votar hoy a favor de esta proposición la verdad es que

de que no quieren ir más allá que el debate necesario debate sobre nuestra organización interna no sirva de excusa para no debatir nuestra

en la que están teniendo lugar en el parlamento un análisis integral de todo el marco institucional vasco

por otro la ponencia de autogobierno y también se está llevando a cabo el debate de tramitación del proyecto de ley municipal de euskadi que culminará la arquitectura institucional vasca y en el cual se incluye expresamente la modificación parcial de la ley veintisiete barra mil novecientos ochenta y tres de territorios históricos a través de su disposición final primera relativa

en el consejo vasco de finanzas o también la modificación parcial de la ley tres barra mil novecientos ochenta y nueve de armonización coordinación y colaboración fiscal

que también aborda la proposición de ley presentada por los socialistas vascos y también hay que citar en este tema los dos proyectos de ley aprobados esta misma semana por el consejo de gobierno

de afrontar la renovación y modernización de la administración pública vasca por lo tanto en este contexto no parece justificado hablar en esta materia de inacciones ni por parte de esta cámara ni por el gobierno vasco con este panorama

y las prisas no son buenas consejeras además teniendo en cuenta que la pasada legislatura

en su calendario legislativo por otro lado y ante las dudas que parecen sembrarse sobre la eficacia y eficiencia del modelo institucional

es de justicia poner de manifiesto una vez más los buenos resultados obtenidos la actual estructura institucional vasca con su fortalezas y debilidades ha dotado

importantes estándares de bienestar y prosperidad muy superiores a los del conjunto de la media del estado español y por encima incluso de estándares europeos y todo ello se ha logrado

quedando pendientes cantidad de transferencias para pasar manos de la comunidad autónoma y nos podemos imaginar cuál sería ese grado de eficacia y de eficiencia

tenemos que expresar nuestras dudas razonables en relación al contenido y la falta de consenso suficiente para poder abordar la reforma que el grupo socialista plantea en primer lugar

sustancial de la ley tres barra mil novecientos ochenta y nueve como la que supondría la aprobación del texto actual de esta proposición de ley deberían ser

y en todo caso parecería más lógico y prudente acometer este proceso una vez sean conocidas las conclusiones de la ponencia de autogobierno y siempre

en segundo lugar creemos que algunos de los contenidos de la proposición de ley tal y como están

no respetan la garantía institucional de la foralidad y el núcleo intangible de la misma derivados directamente

no por el partido nacionalista vasco sino por una consolidada jurisprudencia del tribunal constitucional en tercer lugar a nuestro juicio la redacción actual de la proposición de ley

pues partes muy importantes de la regulación que pretende solamente podrían ser abordados en una reforma del estatuto de autonomía y no a través de una ley ordinaria como la que se propone y finalmente

consagrarían una subordinación de los territorios históricos a las instituciones comunes de la comunidad autónoma lo que

del modelo institucional del país actualmente vigente para lo que no parece que haya el suficiente consenso

a través de una reforma del estatuto de autonomía y siempre con el respeto a la regulación constitucional de los derechos históricos no obstante y a pesar de todas estas salvaguardas el grupo nacionalistas vascos no va a impedir el debate de esta iniciativa en esta cámara por considerar no solo que estamos abiertos

siempre y cuando se respeten las reglas del juego sino además porque somos partidarios del diálogo y el acuerdo como herramienta política básica de la acción pública por lo tanto nuestro planteamiento es muy claro

sí a su toma en consideración pero en cuanto al contenido actual de la propuesta muchas cautelas tanto jurídicas como políticas tal y como

señora presidenta señorías lehendakari consejero

presenta nuestro grupo que presento yo arranca de la interpelación defendida en el pleno

regulación de las cooperativas de vivienda pero va más allá lógicamente también arranca del propio calendario legislativo del gobierno

y también arranca de otras actuaciones del gobierno vasco como es la comunicación que

empleo y políticas sociales en relación con la economía social en dos mil catorce y también arranca esta moción de las propias declaraciones del consejero de empleo y políticas sociales en su momento el señor aburto y también de

la señora ubarretxena y sobre todo esta moción arranca de las necesidades del sector y de las necesidades de ordenar

innovar en la regulación y de adaptarse a los nuevos tiempos en algo tan importante como es ese modelo de economía social emblemático y en cierta

riqueza económica esta moción trata de ayudar al gobierno

que trabaja en un proyecto que tendrá que mandar a esta cámara

de cooperativas que es un proyecto de ley que

lo es también en la concepción que tienen en este momento los trabajos que se están realizando

que es oportuno que es útil o que va a ser útil que va a ser modernizador de ese sector de la economía social que son las cooperativas y que va a ser también

porque busca unificar busca dar una dimensión general a la regulación cooperativas en este caso que es una necesidad que el propio gobierno ya ha identificado y además es que el gobierno vasco cuando aprobó el calendario que ha mantenido aunque

principal de la regulación de una nueva ley de cooperativas

legislativo es la refundición de los diversos textos legales

cuatro barra mil novecientos noventa y tres por razones de sistematicidad facilidad de la

también decía que se precisa una labor añadida de armonización

las cooperativas su gobierno interno todas esas cuestiones que afectan también decía que se innovará en algunos aspectos referidos sobre las infracciones y sanciones también se hablaba de las nuevas cooperativas el cooperativismo de vivienda

otras expresiones del cooperativismo que están deficientemente reguladas en

establecía en su primer momento la fecha de presentación de ese proyecto de ley porque lo consideraban prioritario en el primer semestre de dos mil catorce

las cosas han cambiado el siguiente calendario legislativo ya difería

si se quiere aprobar un proyecto de ley de esas características en una cámara como esta que ya sabemos el tiempo ordinario de regulación de una iniciativa de esas características de un proyecto de ley de esas características complejo

importante ya difería su presentación a primer semestre de dos mil dieciséis

el uno de enero no bien avanzado el semestre de dos mil dieciséis como el propio gobierno

en su página web en irekia y que desde luego establece que este parlamento recogería un proyecto de ley de cooperativas en marzo

y eso impide porque todos sabemos que la legislatura hipotéticamente concluirá después del verano impediría que

que es necesario se convirtiese en una ley también en dos mil catorce el gobierno vasco redactó una comunicación que mandó a este parlamento una comunicación que bueno todavía no hemos debatido porque las comunicaciones se suelen debatir pero bueno dependerá de su tramitación

que hemos exigido al gobierno en anteriores legislaturas sobre economía social pero bueno esa propia comunicación que mandaba el gobierno también hablaba de la necesidad y en concreto

hablaba de la redacción exactamente de una modificación de ley de cooperativas

la razón básica del proyecto legislativo es la refundición también decía ese proyecto esa propia comunicación del gobierno la refundición de los diversos textos legales que han ido modificación la ley cuatro barra noventa y tres

e interpretación coherente del cuerpo legal se innovará en algunos aspectos referidos a las infracciones a la función de inspección

a las nuevas fórmulas de cooperativismo a aspectos puntuales a la transparencia ese es el elemento fundamental ese es el elemento fundamental de por qué nosotros reclamamos esa ley esa ley que tiene que ser importante que esa ley que si viene en febrero o

y eso es una cosa muy seria eso va a formar parte de un incumplimiento del gobierno vasco en relación con lo que tiene que ser propiciar el debate en relación con esas cuestiones y con cuestiones tan fundamentales como esas el proyecto de ley de cooperativas de euskadi desde luego ahora se encuentra según nos dice el gobierno según nos lo ha dicho el consejero y nos lo dijeron en otras iniciativas parlamentarias en una fase de informaciones del gobierno

informes jurídicos dice el gobierno que no será hasta treinta y uno de diciembre la conclusión del debate del debate interno que tiene el gobierno en relación con este tema habiendo tenido ya un borrador funcionando desde hace mucho tiempo entre el uno de enero

de dos mil dieciséis el borrador se encontrará en fase de conclusiones y con posterioridad

para enviar al parlamento estamos hablando de abril marzo se consumirá en las certificaciones correspondientes de los acuerdos del gobierno

aprobación del anteproyecto las publicaciones la remisión al parlamento la publicación en este parlamento ya no estábamos hablando de marzo estábamos hablando de abril

que se apruebe una ley es imposible que se convierta en ley y eso va a ser un incumplimiento

está claro que si el gobierno aprueba el anteproyecto en fechas muy avanzadas

que se ponga en este parlamento será imposible analizar con rigor y aprobar en el parlamento un texto legal ya que la legislatura no aguantará lo suficiente la legislatura después del verano ya sabemos que se ha acabado incluso en el mismo verano o sea que

que para que se garantice una aprobación de una ley de estas características en condiciones debe de presentarse el anteproyecto en el parlamento antes

para que se apruebe con garantías un proyecto de ley y que se pueda trabajar durante el primer semestre precisamente del dos mil dieciséis

las próximas semanas en el próximo mes o a lo largo de diciembre es una regulación la de las cooperativas

debe hacer todos los esfuerzos para asegurar esa tramitación con suficiencia temporal

no nos vamos a creer la voluntad del gobierno vasco en relación con la modificación necesaria esa necesidad de refundición esa necesidad de armonización que el propio gobierno

vamos a entender que no quiere aprobar una ley de cooperativas por eso mismo esa es la cuestión por eso mismo hemos presentado esta moción a raíz además de lo que

interpelación que era un ejemplo de por qué hay que presentar una nueva ley de cooperativas que eran las cooperativas de vivienda comentábamos en la interpelación con el señor toña el otro día cómo se han informado diferentes fuentes de que se está produciendo un auge importante de las cooperativas de vivienda en euskadi se ve la necesidad de elementos de control y figuras normativas

se han detectado determinadas alarmas que hacen ver que es necesario

establecer normas jurídicas en relación con esa forma emergente de economía social y además que con las cooperativas de vivienda con la función social que cumplen además

del observatorio vasco de vivienda dice que las cooperativas de vivienda pueden ser un modelo eficaz y eficiente para la promoción de viviendas de calidad y también constata que existe un elevado desconocimiento entre los socios cooperativistas vamos a darles a los socios también cooperativistas no solamente a los de vivienda sino a los demás elementos

eso es lo que queremos dar con una nueva ley de cooperativas y entonces ese es el elemento fundamental de eso hemos estado hablando ese auge de las cooperativas de vivienda y de otras cooperativas esa necesidad de regulación las alertas que se han abierto en el gobierno

solo una de cada veinte viviendas era de cooperativas en dos mil catorce una de cada tres

funciona a través de cooperativas de vivienda en dos mil catorce se crearon trescientos cincuenta sociedades cooperativas

el consejo superior de cooperativas de euskadi tiene la mitad de las consultas

hay que regularlas el propio observatorio de vivienda del gobierno vasco habla

además dentro del borrador de

respecto a las cooperativas de vivienda a las cooperativas de transporte y a otras cooperativas

pues esas también hay que regularlas y por eso es tan necesario un proyecto

que estimule la creación de empleo que estimule la economía en esa forma de economía social que son las cooperativas

el borrador del proyecto de ley de cooperativas del país vasco habla muy claramente de las necesidades de los porqués por qué es necesario

de cooperativas la necesidad de refundición puede decir de los mencionados textos ha habido

textos y circunstancias imperativos e imponderables también por la trayectoria europea y por necesidades

y hay que cambiar lo que es necesario cambiar sabemos que en esa ley

que tienen que ver con el gobierno de cooperativo con el gobierno de la cooperativa con la situación de los socios

de saber de conocer el funcionamiento interno de la cooperativa que es necesario trasladar a la ley bueno pues eso lo recoge también

el propio borrador de la exposición de motivos de una futura ley de cooperativas

el coste la dificultad de aplicación reforzar la autonomía de regulación

es decir son revitalizar el funcionamiento democrático y participativo de la gestión de las cooperativas del gobierno de las cooperativas son elementos básicos son elementos importantes para dar un acelerón a esa forma

de economía social en este caso que necesita mejores controles que necesita un papel más clarificado del consejo superior de cooperativas que necesita clarificar de verdad las funciones de sanción que no han funcionado en la ley de mil novecientos noventa y tres en relación con los procesos y con las actuaciones

que en ese sentido estamos hablando de una necesidad estamos hablando de una necesidad desde el punto de vista de lo que hay que regular pero estamos hablando de una obligación que tiene el gobierno de un compromiso que tiene el gobierno de un compromiso que tiene el gobierno que no lo puede cumplir en abril de dos mil dieciséis porque sería incumplir

de ley al parlamento de esas características seria incumplir su obligación y la necesidad que ha detectado de reformar y de hacer una ley clara nueva útil innovadora moderna y por eso

de la interpelación en relación con las cooperativas de vivienda pero a raíz de la necesidad objetiva

de la seguridad jurídica del papel del socio ya hemos visto lo que ha pasado con fagor fundamentalmente y con la actitud y con

el gobierno de la cooperativa de no conocer los procesos de decisión de no ser transparentes

solucionar en esta legislatura que ha pasado esa catástrofe económica que ha afectado a la economía social y al modelo cooperativo pues vamos a tratar de darle solución

la ley antes de que finalice este año no lo vamos a dar solución por eso mismo nuestra moción insta al gobierno vasco a presentar en el presente periodo de sesiones el proyecto de ley de cooperativas de euskadi al objeto de que las necesidades normativas de esta forma de economía social donde entre otras se integran las cooperativas de vivienda puedan ser debatidas y aprobadas por la cámara de la presente legislatura

esfuerzo nuestra capacidad de que vamos a ser constructivos de que
amaitzen joan barrio jauna acabo ya señora presidenta de que valoramos positivamente ese borrador que

su papel nosotros le hemos dado un aval a que estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para

en efecto nuestro grupo no ha presentado enmienda a esta iniciativa

no nos ha merecido la suficiente consideración en primer lugar esta moción es exactamente igual a una que se aprobó mañana hace un año

que contó con el apoyo de la bancada nacionalista y que planteaba lo mismo que plantea hoy que viniera para este ejercicio cosa que ya se nos antoja imposible

del grupo nacionalista ya lo fía para el ejercicio siguiente y posiblemente se den las previsiones que usted ha anunciado en esta

y no nos merece consideración la iniciativa no porque no compartamos con usted la preocupación y la sensibilidad por la economía social

es que todos estos clarines y trompetas que anuncian esta ley de cooperativas son para hablar de una ley que en el fondo no plantea tampoco

sí en la exposición de motivos del borrador que se nos envió en su momento efectivamente hay mucha prosopopeya y mucha amplitud

pero si vamos luego a lo concreto a lo concreto veremos que nos dice en esa misma exposición de motivos disposiciones generales

la regulación de la sociedad se mantiene en los términos vigentes los órganos sociales las novedades que se desarrollan son de aspectos específicos aunque la asamblea general se mantiene en su configuración se mantiene

cómo no va a haberlas pero realmente usted ahora coge la percha de cooperativas de vivienda para traer el sí anteriormente trajo una si yo no le niego señor barrio su tenacidad y además la celebro creo que un parlamentario en la oposición tiene que serlo y tiene que hacerlo pero ya ve usted para lo que sirven estos llamamientos

la más cálida acogida a los debates plenarios y al que le deseo éxito en sus desempeños le quiero ayudar en ese propósito no como hace usted

la ley cuanto antes porque no la va a traer nosotros vamos a ayudar al gobierno

apoyando su moción para no agravar la lista de incumplimientos que este gobierno está amontonando entonces precisamente para favorecer digamos que relación de incumplimientos se vaya sumando nosotros nos abstenemos en este punto

no porque no nos parezca importante debatir sobre la economía social sobre lo que es el fenómeno de cooperativas etcétera etcétera

esta moción que trae hoy aquí que sustituía una pnl que hablaba de lo mismo

a esta cámara el proyecto de ley de cooperativas sin embargo lo que se ha traído es un borrador desde hace tiempo y en concreto

la única novedad es que se obliga a la presencia de un letrado asesor porque

garantizar en operaciones inmobiliarias tal pues es en una lectura si se quiere superficial pero para mí suficiente pues es bastante discrecional puede haberlas o no puede haberlas en la exposición de motivos dice que parece necesaria pero luego tampoco impone la obligación dice que

tiempo habrá si es que hay para tratarlo en su trámite de aprobación de las cuestiones más técnicas de ese borrador y qué enmiendas pueden caber pero así en bruto lo que ha venido a esta cámara realmente

no nos ha puesto en pie no nos ha despertado grande emociones

allá para el día de mañana bueno que la traiga cuando tenga que traerla ya la trataremos con suficiente

sí compartimos con usted señor barrio que es una temática de interés no creemos que

el proyecto que aquí llegue que diga grandes cosas

digamos lo que digamos aquí acordemos lo que acordemos esto no servirá de nada es por lo que

efectivamente se ha demostrado suficientemente que no sirve de mucho y que de todas maneras para ese viaje

el repaso la mayor parte del tiempo de su intervención

paseo histórico del cooperativismo

mención a los primeros movimientos ha hecho mención a mondragón

y al cooperativismo en esas localidades ha hablado

también ha hablado del movimiento cooperativo en euskadi como un elemento de referencia nos ha hecho un repaso de la legislación en euskadi en relación con las cooperativas la ley de mil novecientos ochenta y dos y la ley de mil novecientos noventa y tres y su evolución

estamos en nuevas necesidades es decir eso está bien identificar lo que ha sido el proceso histórico económico social pero necesita superar precisamente

y proyectarse al futuro y eso es lo que nosotros entendíamos que podía ser esa nueva ley y que va a ser esa nueva ley y que las necesidades son mucho más importantes que las que yo creo que detecta el propio señor itsaso pero bueno en relación con lo que usted me decía

o sea reafirmar que hay necesidades normativas que se han identificado como importantes y además usted ha hablado del sector y de algunos recelos

no hay que tener miedo al sector señor urrutia hay que pensar en el socio en el socio cooperativista

y en eso yo creo que está enfocado el esfuerzo de o por lo menos el espíritu de lo que tiene que ser la nueva regulación además a la vista

de las cuestiones que han pasado y yo le mencionaba antes el asunto de lo que pasó en fagor

a los representantes de los socios hablando de la falta de transparencia de no un gobierno democrático de la falta de información bueno he puesto a colación

los informes del observatorio vasco de vivienda donde hablaban de la desinformación de los socios de las cooperativas de vivienda pues ese es el elemento fundamental de esta ley el socio el socio no tanto el sector o no tanto la empresa sino el socio que es el elemento fundamental

en esa forma de generación de empleo y de generación de economía y de generación de riqueza ahí es donde nosotros queríamos entender que una nueva ley va a dar

y desde luego sí que es un problema de voluntad es decir si se

el proyecto ley es que no hay voluntad de aprobarlo o sea ese es el elemento fundamental

las necesidades la necesidad de refundición la necesidad de armonización de clarificación de adaptación

pero esa voluntad en el parlamento se concreta en tiempo en tiempo en el que se pueda aprobar y debatir una ley y pensando desde luego

a ustedes que nuestro grupo va a estar proactivo en relación con esas necesidades de la ley nosotros hemos identificado las cuestiones yo le agradezco al señor isasi su actitud en relación con nuestra moción y desde luego que sí

desde luego no tanto del fondo de la cuestión de la vivienda donde las cooperativas de vivienda pues tienen su papel

que usted ha conectado con la necesidad de la reforma de la ley de cooperativas de una nueva ley de cooperativas y que eso es lo fundamental efectivamente

bueno pues de eso se trata también en este nuevo proyecto ley

y al señor urrutia decirle que bueno que esa voluntad se demuestra trayendo

el proyecto de ley yo al señor itxaso sin duda su actitud le va a gustar al partido nacionalista vasco porque el señor itxaso pues no va a exigir al gobierno que traiga el proyecto de ley antes de finalizar

le echa un capote al gobierno me parece bien no me parece bien pero bueno está en su criterio y en su y

cuestiones no son relevantes si el señor itxaso no presenta sus iniciativas parlamentarias y las presentan los demás no son relevantes no son importantes le he visto señor itxaso como pesimista

y yo señor itxaso le aseguro que yo he presentado con el mejor de los espíritus esta moción esta moción que vuelvo a decir tiene como objetivo

de las crisis del modelo a veces y de las faltas de regulación en relación con la información con la participación

dentro de la cooperativas como lo hemos visto en fagor y como nos han puesto de manifiesto algún informe como el que y después las necesidades
de nuevas regulaciones las cooperativas de vivienda transporte junior cooperativas la democratización amaitu mesedez del modelo cooperativo y además

señor itxaso ustedes en gipuzkoa muy bien además muy bien llevado aprobaron al final de

una norma foral de economía social donde donde que nosotros apoyamos

en las juntas generales de gipuzkoa está bien traída pues eso eso ese impulso a la economía social que ustedes

conecta perfectamente con una modernización una clarificación y un impulso a un nuevo cooperativismo que tenga al socio
como centro del sistema y no tanto a la empresa muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

eskerrik asko yo creo que lo primero que tengo que hacer es agradecer las palabras del señor itxaso

y si le vale sepa usted que en lo que hemos tenido ocasión de conocernos yo también le he cogido simpatía

decía el señor barrio que he hecho una evolución historicista y tal

sobre todo lo que trataba de hacer era dar a conocer la evolución de un compromiso de un compromiso que se remonta bastante atrás

que represento ha estado siempre y estará porque como creo que no se le escapa a nadie el sector

bastante difícil y complicado y lo que se trataba de hacer era una unión entre el pasado el presente y el futuro donde estuvimos

yo tengo miedo al sector el partido nacionalista vasco tiene miedo al sector ninguno es al sector

temeroso por la información que tengo

de este proyecto de ley por lo tanto de verdad que miedo

en el tiempo que llevo en esta cámara he podido observar algo que los que saben hablar bien dicen un mantra que es el de acusar siempre al gobierno

de una especie de parálisis legislativa de que todo está quieto etcétera mire yo no me voy a meter

pero creo que esta es una materia y no me malinterpreten lo que voy a decir por favor porque el compromiso está ahí

donde si hubiese un incumplimiento creo que no sería reprochable porque yo no sé si ustedes se dan cuenta de que

estamos tratando de legislar sobre un sector

a punto de caer y que parcialmente lo ha hecho

cuando hablamos de cooperativas o cuando hablamos de economía social no estamos hablando de las sonrosísimas y dignísimas

estamos hablando del grupo mondragón y creo que eso no se nos escapa a nadie y ese buque insignia de la cooperativa y de la economía social

ha tenido un boquete importante en su proa y evidentemente ante eso creo que bueno ciertos temores prudencia

son las que realmente tocan veo que manifiesta usted señor barrio una especial preocupación por el socio

habla de la importancia de la transparencia de la comunicación

lo que pasa es que no se da cuenta de que por ejemplo hemos vivido y vivimos situaciones en cuanto a los socios de la cooperativa

un tema muy espinoso que puede ser muy espinoso en este proyecto de ley que es la responsabilidad de los socios cooperativistas en las deudas sociales yo creo que es

en la comunicación y todo esto creo que estamos todos de acuerdo yo por la experiencia que tengo diría que el partido nacionalista vasco nunca ha tratado de legislar ni para estorbar ni estorbando sino que ha tratado siempre de legislar para impulsar y para ayudar también lo he visto

con el tema de las cooperativas de vivienda mire yo que como parlamentario más novato de esta cámara he tenido que leer bastante

en la tramitación de la ley de vivienda ustedes no tramitaron ninguna enmienda sobre la necesidad de las cooperativas de

recientemente leía una cita de winston churchill que decía que donde se encuentra una voluntad

y yo sé que las tramitaciones parlamentarias suelen ser largas y difíciles pero tal vez todos debiéramos de poner de nuestra parte señor barrio

y deberíamos de desterrar algunas malas costumbres que he observado en alguna otra

tal como el pedir dos plazos de prórroga

en el momento de las fases de elaboración de normas

creo que será posible hacerlo para acabar solamente una pequeña reseña para el señor itxaso y dice que no parece que la ley vaya a impactar mucho en el mundo cooperativo bueno la verdad es que para que no vaya a impactar mucho

un tanto reticente y temeroso sobre la tramitación de la ley en esta cámara eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

tiene una motivación y me parece tan respetable como las que pueda traer yo por supuesto faltaría más lo que pasa es que el valor de las iniciativas también depende como sabe usted

de las leyes físicas de la oferta y de la demanda ustedes han presentado ya esta enmienda por segunda vez y hace bien le reconozco que hace bien y que esa tenacidad y esa insistencia yo la empleo también en aquellos temas que me preocupan lo que pasa es que como le he dicho

no es una actitud pasota es una actitud de cierta rebeldía y dice es que podíamos dicho sí pues claro que la traigan

adoptar acuerdos a sabiendas de que no se van a cumplir pues créame para ese viaje pues no hacen falta alforjas como le digo ha pensado digamos en la segunda parte una cuestión de los socios

todas las cuestiones a tenientes a cooperativas o a economía social

que cuando llegue si llega pues lógicamente tendrá nuestra intervención y nuestras aportaciones y nuestros análisis pero a día de hoy solo contamos con este borrador y dice la regulación

la regulación de la posición jurídica de los socios se mantiene en los términos vigentes singularmente la obligación estatutaria etcétera no sufre alteración alguna el derecho de información de los socios

lo que le quiero decir señor barrio es que claro que hay algunas actualizaciones que serán de interés hombre pues no ha llovido nada desde el noventa y tres y han pasado cosas ciertamente

no es una acusación de retraso es que los hechos son tozudos y hablan por sí mismo es decir el propio gobierno cuando presentó

ya era una moción descafeinada porque lo que planteaba es que viniera en este ejercicio cosa que el consejero ya había prometido por lo tanto ni impulsaba ni controlaba es decir en realidad le daba un poco de aire el consejero ya había dicho que iba a venir fíjense dónde queda el primer semestre del dos mil catorce

la estudiaremos la trabajaremos y pondremos de nuestra parte todo no crea usted que hay una actitud digamos indolente con este tema ni mucho menos lo que pasa es que en fin no resulta plato de buen gusto ponerse aquí estupendo brioso de clamar y proponer cosas sabiendo que

es esta la razón no sé si me he explicado mal ni mucho menos

su iniciativa y su moción lo que digo es que nosotros en aquel entonces teníamos una transacción suscrita

que planteaba que viniera en dos puntos que viniera para el primer trimestre del dos mil quince

y si no puede ser que el gobierno adecue a un nuevo calendario legislativo sus previsiones cosa que tampoco ha ocurrido pero bueno eskerrik asko

kideak quiero expresar un especial saludo

de la sección de las organizaciones sindicales europeas de pesca de la etf de la european transport federation el pasado viernes

una interpelación en cuya defensa recordarán comencé

no era más que la realidad y el ejemplo de que el trabajo en la pesca

con una siniestralidad muy alta comparativamente con otras actividades laborales intenté también

el conformismo irracional ante estos hechos porque se pueden dar pasos para evitar la accidentabilidad y sus consecuencias y no mirar a otro lado como si no hubiera nada que hacer heriotz bakoitzak istripu bakoitzak langile gehiago ez hiltzeko ahalegin

quiero recordar que ayer mismo morían dos trabajadores en santurtzi

con regular una regulación laboral nuclear y fuerte para los trabajadores poniendo medios

garantizando formación y conocimientos con buenas condiciones de empleo luchando contra la fatiga con unos centros de trabajo adecuados con un trabajo en condiciones decentes que eviten que haya más muertos en cualquier tajo y decía también que de esto se trataba lo que el otro día presentaba como interpelación y que de

presenta hoy como moción un acercamiento por vez primera a la dignidad laboral de los pescadores a nivel mundial a través de un instrumento o convenio

internacional del trabajo la organización internacional del trabajo la oit fue creada en mil novecientos diecinueve como parte del tratado de versalles

y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial

había un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social

en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores en los países industrializados de ese momento había también una comprensión cada vez mayor

del mundo y la necesidad de cooperación para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en los países que competían por mercados desde el mismo inicio de la oit se adoptó una resolución por la que se acordaba que las cuestiones relativas a las condiciones

deberían debatirse en reuniones específicas de la conferencia internacional del trabajo que reconocer su globalización antes que el resto de los sectores

requerían de este convenio ciento ochenta y ocho de la pesca de la oit porque el mismo establece un marco básico de las obligaciones de los armadores

obligaciones a los gobiernos para que introduzcan normas en sus respectivas legislaciones los sindicatos están trabajando en cada estado

ciento ochenta y ocho de la oit en la unión europea se ven tímidos avances el comité de diálogo social existente la adopción de este convenio es y lo decía el otro día un homenaje a los treinta millónes de pescadores hombre y mujeres que trabajan en el sector

la oit adoptó en su noventa y seis sesión el convenio sobre el trabajo de la pesca este convenio propone una aproximación innovadora y global en el contexto de la globalización en el sector marítimo

todo lo que integraban los distintos convenios de la oit sobre la pesca

que todos los pescadores a nivel mundial tengan unas condiciones de trabajo y de vida decentes procurando establecer unas normas mínimas aceptables para proteger a los pescadores en todos los aspectos de su trabajo en lo que constituye y todos los sabemos una profesión peligrosa

en este sector el convenio responde a los desafíos que conlleva la globalización con una disparidad de condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques

y control en los mismos para los pescadores el convenio lo hace se establecen unas normas mínimas de acceso en el trabajo en la pesca

así como normas para el trabajo propiamente dicho que incluye desde el contrato de trabajo

el puesto asignado a bordo el importe del salario la finalización del contrato

las vacaciones y la seguridad social y un capítulo sobre seguridad y salud en el trabajo y la prevención de accidentes laborales garantizando la formación básica de los tripulantes en la materia las características mínimas del alojamiento a bordo y la garantía de una alimentación adecuada son también parte de este convenio

es decir el número de tripulantes y su calificación y las horas de descanso son contenidos destacables

se garantiza la capacidad de control del mismo es decir

a las administraciones del estado de bandera del barco o estado de pabellón y por otra parte al estado de puerto que habiendo ratificado el mismo

a todos los barcos que arriben en sus puertos independientemente de la bandera que enarbolen y hayan ratificado o no los estados a los que representan las banderas el convenio la adopción y ratificación del mismo garantiza a los pescadores condiciones de trabajo y de vida decentes y presenta para los armadores la ventaja

al caminar hacia una competencia leal sobre las bases de reglas comunes y controladas y rechazando que llamamos barcos piratas que también existen en la pesca hasta la fecha cuando un barco pesquero arriba un puerto las autoridades marítimas

autorizadas reguladas por la organización marítima internacional es decir la adecuación de los certificados de máquinas puente botes salvavidas etcétera

se podrán inspeccionar las condiciones de vida y contractuales de los pescadores la flota pesquera de la unión europea

trabajadores la flota española cuenta con nueve mil seiscientos treinta y cinco barcos

nuestra flota la vasca apenas tiene doscientos once buques

del total del arqueo bruto y casi un treinta y cinco por ciento de potencia con una eslora media

quiere decir que tenemos una buena flota cercana además

en el mundo internacional o en las aguas internacionales pese a los esfuerzos de la oit apenas se ha avanzado en la ratificación del convenio ciento ochenta y ocho y creemos que desde nuestra comunidad tenemos impulsar la ratificación por los

se pondrá en marcha cuando haya sido ratificado por diez estados de los que ocho deben ser costeros el primer país de la ue en ratificarlo ha sido francia que hace menos de veinte días ha remitido el acuerdo adoptado en su congreso y senado

gran paso de los franceses he de anunciar que hemos logrado al menos que tres de los grupos de la cámara eh bildu

y nuestro grupo socialista hagan un acuerdo en la redacción de la propuesta de la moción nos gustaría no obstante que la votación de esta cámara

sino porque en ella también se reconoce la necesidad de alentar la negociación colectiva que también en nuestra flota en la vasca por su ausencia efectivamente debemos recoger el guante para que la normalidad entre también en esta actividad que tanto décimos admirar

en españa y en euskadi tampoco podemos ofrecernos como modelo de una actividad mientras no se cuente con convenios que garanticen

los armadores de nuestro país en este caso me refiero a nuestro país vasco y comenzando desde los más industriales los de los atuneros congeladores y los de altura

con las organizaciones sindicales la flota vasca tendrá futuro cuando además de creer en la viabilidad económica de la actividad y por lo tanto construir barcos

los jóvenes la contemplen como otra actividad laboral más normalizada en lo laboral crear empleos y hacerlos atractivos a nuestros jóvenes es una asignatura pendiente que la adopción de la moción por todos

aparte de razones de otro tipo voy a ser muy breve y no es una expresión vacía de contenido

y agotan el tiempo hasta poner el marcador en rojo no porque esta moción ya se debatió en forma de interpelación hace escasamente quince días y no voy a entrar a volver

estamos como dijo el gobierno de acuerdo con el contenido del convenio

estamos de acuerdo señor azkue con su moción salvo que en su punto dos

y no a través del gobierno vasco al que con su propuesta convertimos en un mero intermediario en un recadista y no es degradarlo eso es degradarlo y nosotros como comprenderá no estábamos muy de acuerdo estamos de acuerdo en su moción

a los trabajadores residentes en euskadi no hace falta que se lo pida ya lo está haciendo

qué más quisiera este parlamentario su grupo parlamentario y el gobierno vasco que se les pudiera dar lo que pasa es que es una competencia que contenida en el estatuto no se ha transferido y su grupo repetidamente se ha negado a tal transferencia por eso con lo dicho hemos llegado a esa transacción

perfectamente y no voy a reiterar lo dicho por último simplemente recordar

y contiene la condición de que entrará en vigor exclusivamente si diez estados miembros lo ratifican ocho de los cuales además deben ser ribereños lo cual tiene una lógica

o el vaticano que no tendría mucho sentido que yo sepa pasado ocho años de su aprobación solo cinco países lo han ratificado lo que convierte esta moción en el fondo en una especie de brindis al sol

miren pasados estos siete años y visto que muy pocos países lo han ratificado y países de poca relevancia internacional pues uno recuerda

pero solo puede ser vivida mirando hacia delante que es lo que yo creo que tenemos que hacer no obstante yo mismo voy a hacer una trampa

porque usted señor azkue fue viceconsejero de pesca del gobierno vasco y su partido fue responsable de pesca de relaciones internacionales y de la seguridad social

ni al español gobierno se les ocurrió jamás pedir la ratificación de este convenio muchas gracias eskerrik asko tellería jauna